alderdia la historia se repite una nueva iniciativa del partido popular en relación a las ayudas para las acciones locales de promoción del empleo

todos los años este grupo presenta la misma iniciativa poniendo deberes al gobierno para que apruebe

o en su caso también para que resuelva con celeridad dichas convocatorias una vez que se han aprobado berriro

planteamos que lanbide apruebe con carácter inmediato la convocatoria de ayudas de los planes locales y comarcales de empleo del año dos mil dieciséis denok dakigu

pero una vez constatamos la falta de diligencia de este gobierno en relación a los planes locales y comarcales de empleo

a propósito de esta cuestión que ha ido en esta cámara por el partido popular

al parlamento vasco el retraso de la convocatoria de la resolución

publicada el diecisiete de octubre del dos mil trece los ayuntamientos tuvieron un mes de plazo para elaborar sus proyectos

del dos mil catorce lo que tuvo que llevar a que se ampliaran el plazo de ejecución de los proyectos inicialmente previstos para una fecha

hay que recordar como también pusimos de manifiesto el año pasado que también volvimos a traer este debate a esta cámara que el año dos mil catorce ustedes se lo saltaron

en los planes locales y comarcales de empleo se puede decir claramente que fue un año en blanco esa falta de diligencia en la que ustedes sacan tarde las convocatorias resuelven tarde se saltan un año lleva a que los planes locales y comarcales de empleo se solapen y eso que esto era una materia absolutamente prioritaria para este gobierno

el año pasado en el debate que tuvimos en esta cámara berriro ere debate horretan eusko jaurlaritzari

la última resolución del veinticinco de marzo del dos mil quince y también instamos al gobierno vasco a publicar con la debida antelación las convocatorias de que en la medida de lo posible la ejecución pudiera realizarse en el mismo ejercicio

por los informes previos preceptivos pero también quiero recordar aquí que hay una normativa un texto refundido

estatal en relación a la normativa de empleo en la que se dice claramente

tienen que hacer un esfuerzo en que estos planes sean anuales el retraso de la convocatoria de estos planes su resolución conlleva un perjuicio claramente a los ayuntamientos porque muchas veces los planes de los ayuntamientos en relación a actuaciones concretas no se ciñen a un año sino que están también pendientes de la convocatoria del año siguiente y por lo tanto si ahí se interrumpe

pues obviamente hay personas que se dejan de contratar hay personas que no se sabe si se van a poder volver a contratar por lo tanto está acción actitud del gobierno vasco

con una falta de diligencia evidente está repercutiendo claramente en los ayuntamientos

sigue sin aprender de los errores vuelve a caer en los mismos errores y por eso volvemos a traer

en donde instamos a lanbide servicio vasco de empleo a aprobar con carácter inmediato la convocatoria de los planes comarcales de empleo para el ejercicio dos mil dieciséis que no está aprobada ya digo es que la del año pasado la convocatoria se aprobó en marzo de dos mil quince este año llevamos

para cuándo señor consejero para cuándo señor lehendakari la convocatoria correspondiente a este año de los planes locales y comarcales de empleo y del mismo modo planteamos instamos a que se haga un esfuerzo para

la convocatoria de la publicación de estos planes pues a la mayor brevedad posible para que no se solapen se pueda en la medida de lo posible coincidir

natural en definitiva volvemos a instar a este parlamento en una iniciativa por tercera vez que yo recuerde a que cumpla sus compromisos

y eso que el principal problema de los ciudadanos vascos como se ve claramente en el último euskobarometro es el empleo y la crisis económica

que el combatir la crisis económica el paliar los efectos de la crisis económica y el reducir las tasas de desempleo de muchos ciudadanos vascos no está entre las prioridades de este gobierno porque si no no se entiende

este gobierno caiga en los mismos errores un plan

millónes de euros es decir no es calderilla y por lo tanto creo que aquí el gobierno desde el principio de la legislatura porque digo ya son tres años consecutivos en los que este grupo presenta esta iniciativa tenía que haber hecho un esfuerzo mucho mayor

está llevando claramente a un perjuicio a los ayuntamientos que no saben a qué atenerse

para poder desarrollar esos planes que ellos elaboran en cumplimiento de las premisas de las citadas convocatorias y un perjuicio en definitiva para los ciudadanos vascos por eso les volvemos a decir y aprovechando que está hoy aquí el lehendakari alto y claro que basta ya de escapismos

que en materias en las que ustedes tienen competencias propias no las están ejerciendo y lo que más nos preocupa

ya sabemos que todas las políticas que tienen que ver con lanbide tienen un retraso considerable que lanbide se está gestionando mal

en cuanto a la empleabilidad de las personas que las personas que entran en el sistema se les da pocas oportunidades porque el sistema no está funcionando el sistema no está funcionando señor lehendakari y señor consejero

las declaraciones del señor viceconsejero es la resignación de un gobierno incapaz

de hacer frente a los principales problemas que tiene la ciudadanía vasca

luego habla de victimismo pero mientras tanto

de herramientas propias que tenemos en el país vasco como es lanbide el servicio vasco de empleo el señor viceconsejero ha dicho una cosa que yo creo que es vox populi

al principio de su andadura como responsable político en el gobierno vasco ya nos dijo que las empresas pasaban de lanbide es decir que el viceconsejero no nos ha dicho nada que la mayoría de la ciudadanía vasca

tres coma uno doce por ciento según los datos oficiales la cantidad de cobros indebidos ciento veintiocho millónes

cómo lanbide es incapaz de seguir un itinerario formativo para que esas personas que entran en el sistema salgan porque ese es el objetivo de lanbide señorías ese es el objetivo de una herramienta que tenemos los vascos y tenía que haberse puesto por parte de este gobierno sin ninguna duda

y nos preocupan que esas declaraciones se hagan desde la resignación de un gobierno que tira la toalla de un gobierno que no pone soluciones en la gestión de un organismo clave para luchar contra la crisis económica

y para todavía paliar las cifras de desempleo que tenemos en nuestra comunidad que muchas veces decrecen a un ritmo inferior a lo que lo hacen

luego viene el señor lehendakari y se mete continuamente con el gobierno central pues menos mal que están las medidas del gobierno central porque las herramientas que ustedes tienen en su mano ya vemos

nada y encima tenemos miembros del gobierno como fue en su momento el propio consejero cuando dijo que las empresas pasaban de lanbide o cuando ahora ha dicho el viceconsejero

eso es una realidad que ustedes mismos reconocen qué va a hacer señor lehendakari qué va a hacer no se ría yo creo que no es un tema para reírse yo creo que no es un tema para reírse viendo la ingente cantidad de recursos económicos que tiene

políticas de empleo por eso creemos que tendrán que asumir alguna responsabilidad ante esta gestión tan desastrosa

de pedir la dimisión de una persona que puede estar bien no se si corresponde o no veremos a ver cómo asume el lehendakari esta responsabilidad de tener

que no cumple sus cometidos que es incapaz de gestionar las ayudas sociales

que es incapaz este gobierno de cumplir los objetivos que se fijaba el señor aburto de llegar a un cinco por ciento que luego el consejero nos dice que las empresas pasan de lanbide

nos preocupa la responsabilidad que asume pero este lehendakari

de todos los vascos y como el responsable máximo de este gobierno y hoy la iniciativa que traemos a este parlamento es un ejemplo más

de los planes locales y comarcales de empleo que por tercer año consecutivo le tenemos que decir al gobierno que haga y que cumpla los compromisos adquiridos

por esa inacción por esa pasividad por esa apatía por esa falta de liderazgo y ambición estamos perjudicando a los vascos por lo tanto señores

en políticas prioritarias no nos venga luego hablando de gobierno para las personas pero dónde están las personas para este gobierno dónde están las personas para este gobierno

que ponga en marcha los planes locales y comarcales de empleo que resuelva las convocatorias de los planes locales y comarcales de empleo

hasta cuándo señores hasta cuándo señor lehendakari hasta cuándo señor consejero espero que

acuerdo en relación a algunos puntos de la enmienda presentada por parte de eh bildu y otra vez se verá en esta cámara la soledad de este ejecutivo

no son las personas y la principal preocupación de los ciudadanos vascos que es el empleo eskerrik asko

que marca la resolución hay que decir que el cumplimiento de todos los porcentajes en ocasiones

tanto a las agencias de desarrollo como a los ayuntamientos a la hora de poder tramitar o gestionar o dirigir estas contrataciones o estas ayudas puede ser que una persona tenga

una persona la capacitación que se requiere de una persona justo la persona que cumple esas funciones

colectivos que se exige y también puede ser que

dar o contratar a la persona que en cuanto a ingresos o

en cuanto a las necesidades más necesitada pueda estar pues tampoco se cumpla pongo un ejemplo

el treinta por ciento de los perceptores que tienen que ser de la rgi eso no significa que por ser perceptor de la rgi no haya otras personas que tengan menos ingresos pero que

de los tres años de empadronamiento por poner un ejemplo pues no puedan acceder simplemente por poner un ejemplo entonces sí que es verdad que en cuanto a la baremación y tal es positivo que se prioricen los colectivos

pero es verdad que esto luego pues encorseta mucho por ejemplo en cuanto a la duración de las convocatorias

y además hay que tener en cuenta también que las convocatorias no siempre salen en la misma fecha como lo ha dicho laura garrido el año pasado se publicaron el treinta y uno de marzo

todavía no se ha publicado con lo que las agencias de desarrollo local y los ayuntamientos también se les hace imposible una planificación

algo también por una parte incoherente porque supone que estas ayudas son ya para desarrollar las acciones que se enmarcan en los planes comarcales estratégicos

lituzkeenak y bueno pues aprovechando que está aquí el señor consejero que todavía no ha salido esa resolución pues sí que solicitamos directamente que se incorporen por lo menos algunas de estas propuestas que además

propuestas de eh bildu sino que también muchas de las agencias de desarrollo son propuestas

direlako sabemos que parte de la labor de la oposición es criticar al gobierno y eso ustedes lo saben hacer muy bien pero lo mismo que achacan a la falta de iniciativa pasividad

los malos datos del paro deberán también reconocer su trabajo y los efectos positivos de su labor cuando los datos del desempleo y la reactivación económica mejoran como bien saben desde el inicio de la legislatura el gobierno tiene marcado como primer eje de su labor el empleo

generación de empleo se han ido aprobando diferentes planes como medidas concretas con medidas concretas y evaluables dentro de ellas tenemos

del empleo para atender las necesidades locales del empleo de cada ámbito territorial y especialmente

esto va un poco en consonancia con el punto primero de la enmienda de adición de euskal herria bildu se persigue

definiendo un modelo de intervención flexible ajustado a la realidad social y económica local

por lo que la distribución del presupuesto entre las diferentes comarcas y municipios

en función del índice de desempleo de cada uno de ellos en el momento de la convocatoria

da bete es imposible realizar la convocatoria resolución y desarrollo en un mismo ejercicio por el propio funcionamiento de la administración señora garrido primero

que como usted bien conoce es a finales de diciembre habilitar

de la oficina de control económico y aprobación en el consejo de gobierno para lo cual son necesarios como mínimo dos meses posteriormente

un mes más para la presentación de proyectos un periodo de hasta seis meses para la resolución de los mismos por parte de lanbide dependiendo de la entidad de los proyectos contratos a las personas desempleadas con una duración que oscila como decía también la señora zulaika entre los tres y seis meses siendo la duración de mala mayoría de seis meses

se han de justificar por parte de los contratantes en el plazo de tres meses desde la finalización de los contratos el pago se realiza entre uno y dos meses a contar desde el plazo anterior todo el proceso dura dieciocho meses por lo tanto lo que solicita el partido popular en su punto segundo es un brindis al sol imposible de cumplir material

es como si pidiéramos al gobierno que haga coincidir un curso escolar con un único ejercicio imposible verdad pues en este caso ocurre lo mismo

aldatzeko pero nos parece fuera de todo rigor jurídico solicitar la aplicación de

independientemente de que continúe en vigor horretan esan bezala ez gaituzue

es que para que lanbide proceda al pago de las correspondientes cantidades el salario abonado

siempre ha de estar justificado que así ha sido

debe estar por encima del salario mínimo interprofesional besterik ez mila

maneiro jauna zurea da hitza únicamente para decir que votaré a favor de la propuesta original de la señora garrido gracias eskerrik asko

en este punto nuestro grupo no ha presentado enmienda

versa sobre una cuestión que es reiterada que es redundante porque se ha planteado como ya se ha dicho en otras ocasiones por lo tanto estamos ante más de lo mismo o llueve

vamos a apoyar por tanto la iniciativa planteada y apoyaremos también el primer punto de la enmienda de adición

que el gobierno se ha centrado fundamentalmente en la reactivación económica

recordar que fue el mismo consejero el que no hace tanto tiempo declaraba que lamentablemente el crecimiento económico

lo dijo el propio consejero y por lo tanto el afán del gobierno por reactivar la economía que va de suyo muy bien muy loable

para la creación de empleo posiblemente las políticas de empleo por sí mismas tampoco crean empleo pero son acciones y actuaciones obligadas en todo caso

en todos los debates que sobre este particular ha tenido lugar que entendemos que las políticas de empleo y lo hemos dicho en alguna otra ocasión de forma muy ritual es un hijo no deseado el gobierno las políticas activas de empleo ya desde la transferencia las ha entendido de una manera en fin un tanto desigual

de hecho tenía en su calendario legislativo una iniciativa que era la ley de empleo que la marcaba además con un asterisco como una actuación importante dentro del calendario legislativo

y bueno planteó que querían hacer una cosa mucho más en fin

hay una ley de empleo sí una ley de empleo básica del estado

diferentes versiones la última es el texto refundido de la ley de empleo el real decreto legislativo tres barra dos mil quince donde en el artículo cinco dice instrumentos de la política de empleo a intermediación laboral

y c coordinación entre políticas activas y protección al desempleo lo que nosotros vemos es que el gobierno a lo que le presta mucha atención es a las políticas pasivas y además vemos que en fin la dificultades de gestión pues tampoco con éxito hasta el momento porque ya sabemos que también

el célebre asunto de los pagos indebidos y demás en materia de políticas activas de empleo

una de ellas los planes locales y comarcales porque para las estrategias de empleo efectivamente la cuestión de la dimensión local tiene mucha importancia y suscribiendo plenamente lo que se ha dicho por parte de la señora garrido por parte de la señora zulaika

no cumplen con otro de los cometidos que plantea este texto refundido el artículo once que habla de planes anuales de política de empleo es decir hay un principio de anualidad de esas políticas pero el gobierno consigue acaballar entre diferentes ejercicios presupuestarios vaya a usted a saber con qué intención de manera que

una ampliación de los tiempos y de los plazos con las consecuencias ya descritas por los anteriores intervinientes

sectorial a cada una de las políticas activas de empleo y ver efectivamente

por dónde cojean pero bueno se dirá que igual ese no es el objeto del debate y por lo tanto pues igual omito todo comentario pero sí que estaría bien hacer un repaso de ese tipo porque en el tema de orientación pues las convocatorias también se han ido retrasando

con la formación ocupacional ha habido una reducción del quince por ciento pasando de entre nueve y doce euros por alumno ahora a seis y ocho

es que las agencias de desarrollo no son más que negociados municipales que mancomunan las mismas

reconoce como beneficiarios directos entonces tienen que hacer convenios de colaboración que es una cosa un poco extraña con los propios ayuntamientos que están en sus consejos de administración es decir en todo esto vemos que falta punch y si

cinco donde habla de la intermediación laboral pues el propio gobierno ha dicho lo que piensa sobre la intermediación laboral hace escasas horas

con suficiente notoriedad como para considerar que efectivamente el gobierno no solo ha tirado la toalla sino que es casi imposible cualquier intento de reanimación

que sería en fin en los mismos términos que la propia iniciativa porque la iniciativa lo que hace es recoger ya acuerdos anteriores es decir más y más y más de lo mismo

que el gobierno coja brío o realmente se active porque la inercia alcanzada nos lleva a pensar que esto va a ser así no obstante

la oposición está en esta cámara para hacer lo que corresponde a un parlamento y es controlar e impulsar la acción del gobierno en este caso controlar para ver

su falta de diligencia en cuanto a concretar esos planes locales y comarcales de empleo en un principio de anualidad

el gobierno incluso con acuerdos aquí adoptados en los que la bancada nacionalista a suscrito como va a pasar hoy con el punto uno pero no cambiará el estado de las cosas por lo tanto nosotros

tenemos que seguir haciendo lo que se espera de un grupo de oposición controlar e impulsar la acción del gobierno criticar

y lo hace el gobierno y lo hace cualquier otro grupo tanto si apoya al gobierno como si está en la oposición el análisis crítico es muy importante para la higiene y para la salud mental y por supuesto para el debate político

pero es que aquí estamos haciendo algo más que criticar estamos poniendo de manifiesto que efectivamente en esta cuestión concreta que aquí se trae

vemos que hay quejas importantes por parte de las entidades colaboradoras no solo las agencias de desarrollo comarcal sobre las que ya he hablado hay otras entidades colaboradoras de carácter privado que se encuentran en esta situación descrita por ejemplo forem ha tenido que cerrar es decir la incertidumbre que crea el gobierno

a las entidades colaboradoras sean públicas o privadas a situaciones de incertidumbre pues poco deseables por lo tanto lo dicho

la tercera ya que se plantea en estos mismos términos y apoyaremos el punto uno

la cuestión es que estamos ya al final de la legislatura y demasiadas ocasiones y por demasiadas veces

a este gobierno algo que tenía que haber sido obvio para cualquier gobierno que nos lo decía al principio de la legislatura y continuamente

públicas y comparecencias de todos los miembros del gobierno que lo importante para el gobierno eran las personas lo hemos visto

sobre todo en materia de políticas sociales y empleo que no ha sido así también tengo que traer aquí a colación cómo este gobierno cerró el grifo de las ayudas a la conciliación

en un acto de absoluta propaganda y propagandístico diciendo que va a aprobar para el año dos mil dieciséis

políticas y cumplir los compromisos en materia de conciliación de la vida laboral familiar y personal de las familias vascas ustedes

las que este grupo ha traído esta iniciativa al parlamento vasco por su inacción pasividad atonía

no sé qué les pasa porque es que la competencia es de ustedes se pasan el día reclamando competencias

y para una competencia que tienen que es fundamental hace aguas por todos los sitios ya no digo que hagan cosas nuevas

las previsiones concretas que ustedes tienen encomendadas en su programa de gobierno en su calendario legislativo en sus propias comparecencias son incapaces de llevarlas a efecto un gobierno

en las políticas que tienen que ver con las personas con las familias vascas la política social las políticas de empleo y obsesionado y empecinado eso sí en las cositas de siempre que son cosas del pasado y que aburren desde luego nos aburren mucho a los vascos y desde luego que no aparecen en las primeras posiciones y ya muy lejos en todas las encuestas que se hacen a los ciudadanos vascos

tenían que haber sido una prioridad para este gobierno y no han sido una prioridad para este gobierno es que no ha sido una vez es que han sido tres veces a día de hoy

le tuvimos que recordar que resolvieran la del dos mil quince

también les tuvimos que recordar porque es cuando también lo vimos que en el año dos mil catorce se habían comido una convocatoria

esto debería de ser una prioridad para este gobierno lo que no entendemos no es que no alcanzamos a comprender cuando ustedes tienen competencias tienen herramientas tienen lanbide con todo el presupuesto que tiene lanbide con todo el personal que tiene lanbide pero qué están haciendo ustedes en lanbide

sociales gestionan tan mal que tienen una cantidad de cobros indebidos que luego son tampoco incapaces de recuperar

nada de nada pero qué están ustedes haciendo no intermedian

lo que pasa es que lo que no puede ser es que su incapacidad para gestionar el servicio vasco de empleo lanbide repercuta en todos los vascos repercuta en los ayuntamientos vascos en este caso sin poner en marcha un programa esencial como son los planes locales y comarcales de empleo es que se lo tienen que hacer pensar muy bien porque desde luego esto denota claramente el gobierno y este gobierno lo que da de sí y finalmente

para una cuestión que no legislan porque ya nos dijeron que la ley de empleo no venían una ley prioritaria que venía en el calendario legislativo hombre pues podían fijarse en algo muchas cosas positivas que se han legislado a nivel estatal doscientos cuarenta y cuatro leyes por cierto de las que ustedes solo han recurrido

de ser y les han venido muy bien pero podían fijarse en alguna de las previsiones que se contenían en esas leyes o que se contienen de hecho en esas leyes como el real decreto ley al que se ha hecho referencia tres barra dos mil quince de veintitrés de octubre

y ahí se habla de la anualidad de las políticas de empleo por lo tanto señora arregi

de la que está claro ha carecido a lo largo de toda legislativa y una prueba más es la inacción en esta materia de empleo y en este asunto que hoy hemos traído a esta cámara en los planes locales y comarcales

oso argi zer esan nahi dugun gure zuzenketarekin en el primer punto en lo que nos referimos a hacerlo en base a las necesidades y características de cada zona y junto con todos los

no solamente nos referimos a que se de más dinero a aquellas zonas en las que

para intentar desequilibrar esas tasas sino que se haga conjuntamente con todos los agentes socioeconómicos y teniendo en cuenta las necesidades reales y luego como hemos dicho un poco o hemos intentado trasladar en la primera parte

las agencias de desarrollo bien las mancomunidades son quienes tienen que tomar un papel referente en la gestión

tenga más dinero si luego entre los propios ayuntamientos de la comarca ni cotejan ni se ponen de acuerdo a la hora de tramitar estas ayudas que se hagan

estratégica de la comarca eso es lo que queremos decir con ese primer punto

no tratamos de pedir nada ilegal sino que intentamos que de alguna

como son en este caso de alguna forma intentar blindar que tengan unas condiciones dignas cuando hablamos de que sea empleo digno no solo nos referimos a un salario que por lo menos para eh bildu no sé si para vosotros sí pero para eh bildu un

pero vamos más allá nos referimos a unas condiciones establecidas por unos convenios pues de permisos de seguridad en el trabajo y demás que se cumplan unas condiciones dignas hemos visto

más allá únicamente de tener en cuenta ese salario que como digo para nosotros

no tendría que ser y siempre eso teniendo en cuenta

como mínimo pues el por tener una referencia es decir se podrían poner otros datos u otros

de duración del contrato se podría poner otros salario mínimo pero por tener una referencia creemos que lo más justo es tener en cuenta la referencia

en sus convenios que se apliquen lógicamente esas condiciones yo no creo

nada ilegal y bueno sí que pediría la portavoz del pnv sí que ha dicho que por lo menos el primer punto va a votar a favor

creemos que mejora sustancialmente o que mejorarán en su caso si el gobierno tiene a bien cumplirla pues estas convocatorias

esto para hablar un poco de todo desde las ayudas a la conciliación a las declaraciones ayer del viceconsejero

mire de la ley de empleo también ya hemos dicho y no nos cansaremos de repetirlo por aprobar o traer una ley de empleo aquí se consiguiera solucionar la situación de desempleo en la que se encuentran todas las personas que están en esa difícil situación

más de una ley de empleo y de todas formas como usted

aprobación o no de una ley de empleo no es la varita mágica

tristemente se encuentran tantas y tantas personas porque si no

a que usted estaba alabando no habría la situación las tasas de desempleo que hay en el estado que están por cierto bastante por encima

que en euskadi por lo tanto tanta pasividad apatía tirar la toalla no parece que los datos

es gratuito pero los datos no avalan lo que usted están diciendo

trabajo de tirar la toalla se está produciendo en el estado pero desde luego aquí en euskadi no el gobierno

trabajando y usted dice que se han dejado de poner en marcha

y no es cierto todos los años se ha sacado la convocatoria y todos los años se ha resuelto y todos los años se han

entes locales para que puedan contratar a personas en su ámbito y así se hará este año también

pero usted siga y ustedes pueden seguir pidiéndolo las veces

pues será imposible se sacarán y no tenga la menor duda que se va a hacer y que se va a hacer antes de que se acabe este periodo

y lo que tampoco voy a admitir es que unas palabras desafortunadas que han sido tachadas de desafortunadas por el propio consejero por las palabras que dijo el viceconsejero

que han sido tachadas de error de equivocación que eso vayan a empañar toda la labor de lanbide porque no todo está mal en lanbide ni mucho menos se ha mejorado poco a poco pero se ha mejorado se ha aprobado

incluso esto ha sido valorado positivamente

y aquí quizás conviene recordar y mencionar en qué situación se encontraba lanbide cuando este gobierno tomó las riendas ya saben de aquellos polvos estos lodos se acuerdan verdad de quién puso en funcionamiento lanbide y con la ayuda de quién

tenemos la competencia de las políticas activas de empleo que tanto que sean transferidas y también tenemos a lanbide por lo tanto trabajemos todos y todas para que lanbide se convierta en la intermediación laboral en euskadi entre empresas y entre personas buscadoras de empleo para ello lo que necesitamos es que todos rememos en la misma

contestado a la señora garrido usted también la mencionaba señor itxaso y

ya hemos visto por parte de los grupos de la oposición que en esta materia al menos el gobierno

que usted acuda como argumento recurrente al hecho de que esta transferencia vino con el gobierno anterior y que el problema

hombre pues no nos parece que sea la mejor defensa para la acción de gobierno porque esta es una legislatura que se va a completar y desde luego tiempo ha habido

en segundo lugar debo decirle que gracias gracias al papel que jugó entonces su partido lanbide fue un autentico punching ball porque no pudo venir la transferencia

luego llegó a través de una gestión que hizo su partido a través de un arreglo con los presupuestos generales del estado

supuestamente trayendo aparejado una mercancía no averiada

fueron ochenta y ocho millónes de déficit en un ejercicio y cuarenta en otro esa mercancía que estaba averiada

decirle que bueno que las palabras del viceconsejero no han sido desafortunadas ha sido realmente lo que piensa el gobierno

y franqueza y eso no puede tener reproche claro lo que pasa es

públicamente hable en esos términos desdeñosos

nos parece que no es que sea desafortunado es que realmente es

confunde la constitución de mil novecientos setenta y ocho con el fuero de los españoles

no lo digo como mera ocurrencia está claro que

pero es que además como aquí se ha dicho el gobierno del partido popular está recurriendo absolutamente a todo se ha lanzada a una cruzada contra

y contra la garantía del derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones del artículo dos una cruzada al grito de mariano y cierra españa por la cual realmente la competencia autonómica que en este caso es exclusiva como ya se ha dicho en materia de vivienda se pretende directamente vaciar de contenido tengo que reconocer que el recurso como tal y los documentos que lo acompañan pues han llegado

escasas horas y por lo tanto no he tenido ocasión de hacer pues en fin una lectura

intentar adentrarme en digamos los contenidos tiempo habrá para ello pero sí decir que los argumentos

el recurso del gobierno de españa parten ya de una presunción que la ley en ningún momento la ley de vivienda en ningún momento

porque en un informe preventivo que ya mandó el gobierno español cuando se estaba al comienzo de la tramitación de la ley ya venía anunciando además

atándonos los machos y por lo tanto el gobierno ya venía planteando eso y en base a qué lo planteaba es que la ley vasca de vivienda pretende nada menos que definir el contenido esencial de la propiedad claro

sí es verdad que el decreto andaluz recurrido en su momento empezaba solemnemente diciendo eso que venía a definir el contenido esencial de la propiedad

en ningún momento hace en ningún momento dice que venga a definir el contenido esencial de la propiedad lo que viene a decir es que quiere definir la función social de la vivienda que esto es también otro precepto constitucional el treinta y tres

pero no obstante no obstante todo esto se hace

y que nadie puede ser privado de sus derechos y bienes sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social

la ley de vivienda en definitiva lo que plantea es por ejemplo en relación a la vivienda deshabitada

el propio consejo de estado se lo recuerda pero en fin la ley de haciendas locales que tiene ya larga data en relación al capítulo relacionado con el impuesto de bienes inmuebles

de imponer por parte de los ayuntamientos un gravamen a las viviendas vacías otra cosa es que el legislador estatal en este caso tampoco desarrolló reglamentariamente qué es vivienda vacía y es verdad que termina por ser un concepto jurídico indeterminado salvo cuando un reglamento el que tenga que hacer el gobierno termine

qué es una vivienda vacía pero no es un cuerpo extraño que se grave que se tenga en cuenta

tal y como dice el artículo cuarenta y siete de la constitución de que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada

el estado que no tiene competencia en la materia solo puede ser por ley autonómica aquí en navarra en canarias en todos esos sitios donde

decía una cosa que es verdad y es que le llamaba la atención que la ley de vivienda de cataluña que tiene un alcance parecido e incluso señalaba que mayor que el nuestro no ha sido recurrida por lo tanto

en fin con una cierta venalidad porque si hay otras leyes sectoriales de vivienda

eso quiere decir que es que no se basan en fundamentos jurídicos sino en cuestiones o en criterios de oportunidad política

no podíamos por menos que suscribirla nos parecería interesante que esta iniciativa que ha sido

el máximo consenso de esta cámara porque estamos hablando de contenidos esenciales

no de la propiedad son competencias que tiene nuestra comunidad autónoma y otras que también han legislado en esta materia y que han sido recurridas por lo tanto se trata de defender nuestras competencias no hay ninguna invasión competencial porque claro luego cuando habla de además en una comprensión también poco que he visto muy superficialmente dicen hombre es que la ley quiere definir la función social en qué quedamos

claro por otra parte residenciar esto en el tribunal constitucional hoy en día tampoco es que ofrezca

muchas garantías de imparcialidad o de independencia siquiera verdad entonces

entonces claro este recurso recurso además en el último momento o sea en el tiempo de descuento

en funciones y supliendo al presidente señor rajoy la vicepresidenta quiero decir que también

porque tiempo ha habido para haber recurrido hasta el punto de que el gobierno anunció la eventualidad de recursos a poco que se inició

de ponencia la señora llanos nos decía la semana pasada a propósito de esta ponencia y lo decía además de manera también un tanto despectiva

en interminable debates filosóficos y demás

su antonomasia la actividad del un parlamento legislar

y precisamente legislar entraña una responsabilidad entraña realmente una cierta complejidad

precisamente tenían en cuenta los apuntes que ya el gobierno español venía haciendo en sus diferentes informes sobre el propósito de recurrir al constitucional fuera cual fuera el resultado final de la ley en materia de expropiación o las figuras más intervencionistas

es algo que le corresponde al estado etcétera y sin embargo todas esas figuras

tienen un carácter excepcional y es una intervención que queda supeditada siempre como cláusula residual a la ausencia de solución habitacional porque si en constitución dice que todos los españoles tienen derecho a tener una vivienda digna y adecuada y que además para ello los poderes públicos deben promover las condiciones

pues esto es lo que ha hecho esta cámara tratar de promover las condiciones necesarias teniendo muy en cuenta los argumentos que en su momento dio el constitucional al decreto de ley andaluz

de solución habitacional porque si debe de tener preeminencia la normativa del estado y esa suspensión de los desahucios y todas aquellas

bien que las tenga por lo tanto no habrá problema de solución habitacional y entonces no operaran esos artículos solo operarían en última instancia

y en un momento dado una persona o una unidad convivencial se ven arrojada a la calle porque lo que no me negarán ustedes señorías es que para un artículo tan solemne como el artículo cuarenta y siete que plantea esos en los principios rectores de que todos

que es bastante paradójico que con una declaración tan solemne hayamos podido ver en los últimos años precisamente como ese derecho no tenía lugar y como más bien ocurría todo lo contrario no por lo tanto esa ley ha tenido entre otras

previsiones la de precisamente tratar de conseguir ese principio constitucional sea una realidad por lo menos dentro de lo que es nuestro

desgraciadamente nuevamente sobre la ley de vivienda y digo desgraciadamente porque lo óptimo hubiera sido que esta ley de vivienda

inmediata pero lo cierto es que por unos o por otros lo cierto es que todavía esta ley de vivienda digamos que no está siendo aplicada con lo cual este debate

y no tenemos otra opción que seguir defendiendo los contenidos esenciales de esa ley de vivienda que nosotros mismos con nuestro único voto hicimos posible

la ley de vivienda este asunto a propuesta de eh bildu y en relación a la suspensión cautelar de la ley por parte del tribunal constitucional una vez admitido a trámite el recurso del gobierno de españa el tribunal constitucional ha dictado una providencia en la que admite a trámite el recurso y suspende la ley

la ley de vivienda no estará en vigor y durante los cuales podrá decidir sobre el asunto el tribunal constitucional anuncia que dará traslado del expediente tanto al gobierno vasco como al parlamento vasco al objeto de que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular

convenientes y a partir de ahí y de estos argumentos la propuesta de eh bildu digamos que nuestra enmienda de totalidad es más política jurídica porque creemos que el tema es sobre todo político creo que la enmienda de totalidad de upyd es clara proponemos que este parlamento se reafirme y revindique nuevamente el derecho subjetivo

derecho recogido en la ley de vivienda que pretende hacer efectivo el derecho a la vivienda recogido en el artículo cuarenta y siete de la constitución española la ley de vivienda reconoce el derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna

ante el departamento competente en materia de vivienda del gobierno vasco y que las resoluciones de esta administración serán recurribles ante la jurisdicción contencioso administrativa la ley de vivienda con el reconocimiento efectivo del derecho subjetivo a una vivienda digna y adecuada hace que en nuestra opinión efectivo y real y reclamable el derecho

para que de este modo uno de los derechos esenciales recogidos en nuestra constitución no sea una simple declaración de intenciones sin efectividad práctica

un derecho y al ser este tal significa que esta titularidad está reconocida por el estado entendido este como el conjunto de los poderes públicos la legitimidad para ejercer el derecho subjetivo se refiere al conjunto de condiciones que la norma objetiva exige a los sujetos que pretendan acceder a él y disfrutarlo

en su contexto con las demás del ordenamiento jurídico la que indica los requisitos que debe reunir la persona para que por sí misma pueda tener la legitimidad que la ley exige para ejercer válidamente su derecho la ley de vivienda constituye

nos sentimos orgullosos de nuestro voto decisivo y hoy volvemos

la marea reaccionaria y pase un tiempo esta ley de vivienda pese a todos los defectos de los que pueda adolecer será ejemplo para otras comunidades políticas la consideración como derecho subjetivo del acceso a la ocupación de una vivienda digna y adecuada contribuye a cerrar un círculo que

se refiere el derecho a la salud a la educación a una renta de garantía de ingresos y el derecho a la ocupación de unavivienda digna son los pilares de una sociedad democráticamente avanzada es normal porque así ha sido siempre que ante

haya que enfrentarse con quienes tienen pavor a la extensión y al fortalecimiento de los derechos sociales en este caso es evidente que está ocurriendo

realmente no sé qué es peor si las trabas del gobierno de españa intentando evitar que esta ley de vivienda pueda finalmente aplicarse en euskadi y extenderse después al resto de comunidades autónomas o las trabas del partido nacionalista vasco ciertamente más sutiles y elegantes

vía tratar de meter miedo a los ciudadanos y mentir sobre su contenido real recordemos aquellas declaraciones del portavoz del gobierno sobre el efecto llamada que esta ley provocaría o sobre la catástrofe presupuestaria que esta ley provocaría o sobre los recortes sociales que

y trabas también digo con posterioridad a su aprobación vía proyecto de decreto

limitar el alcance de la ley por lo tanto no sé que es peor si las trabas del gobierno de españa o las trabas del gobierno vasco y del partido nacionalista vasco en todo caso queda claro que tanto al partido popular como al partido nacionalista vasco esta ley les queda grande porque

pretende hacer realidad un derecho reconocido en la propia constitución española como es el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada en nuestra

respetaremos esta ley es una buena ley porque es una ley necesaria para la inmensa mayoría de los ciudadanos y porque plantea soluciones reales a un problema gravísimo como es el de la falta de vivienda y

y más allá de que respetemos y acatemos lo que el tribunal constitucional finalmente señale

respetaremos y acataremos lo que el tribunal constitucional finalmente diga esta es una ley en nuestra opinión perfectamente constitucional lo que debería ser declarado inconstitucional es por ejemplo que el gobierno vasco disponga de viviendas vacías

en la calle esto sí que tendría que ser ilegal e inconstitucional

al acceso a una vivienda digna y adecuada es una ley que establece determinadas medidas que evitarían desahucios

centenares de ciudadanos vascos y es una ley que establece que todas las viviendas públicas deben ser de alquiler por lo tanto plantea en nuestra opinión

razonables por tanto más allá de que reconozcamos el derecho del gobierno de españa a recurrir leyes de este parlamento y más allá de que debamos acatar

como una ley que creemos constitucional además de avanzada

justa y necesaria para los ciudadanos no se trata tanto en este caso de defender el autogobierno

una ley que consideramos útil justa y necesaria en relación a los conflictos competenciales que se están multiplicando en los últimos tiempos entre el gobierno de españa y el gobierno vasco más allá de echar la culpa a un gobierno creo que esta multiplicación de conflictos competenciales evidencia

está fallando y que por lo tanto hay que proceder a una reforma constitucional para poner orden en todo esto de tal forma que las competencias del gobierno de españa

y también queden claras cuáles son las competencias del gobierno vasco creo que es normal que en una democracia haya conflictos entre gobiernos

es que haya conflictos todas las semanas entre el gobierno vasco y el gobierno de españa ciertamente en muchas ocasiones es consecuencia de las medidas adoptadas

de buscar culpables se trata de impulsar una reforma constitucional para que queden las competencias que corresponden al gobierno de españa y las competencias que corresponden al gobierno vasco esto creo que se corrige con una reforma constitucional

simétrico y solidario creo que esto es lo que debería hacerse realmente esto es lo que pensamos que necesita españa y por cierto no un estado federal asimétrico

o confederal sino un estado federal simétrico y solidario con competencias claras en un gobierno o en otro creo que de esta forma nos ahorraríamos muchos problemas

si todos ustedes sacaran sus manos del tribunal constitucional también sería una buena medida de regeneración democrática es decir

por ustedes es decir por los partidos políticos mayoritarios creo que también es una medida apropiada una medida de regeneración democrática que sin duda

y el tribunal supremo y el consejo general del poder judicial ustedes pueden hacerlo en el congreso de los diputados esperamos que cuanto antes

decir que estoy en general de acuerdo con la intervención del señor itxaso especialmente cuando ha recalcado el carácter excepcional

en esta ley de vivienda y que ciertamente han sido propuestas polémicas creo que es importante señalar eso que todas ellas tienen un carácter excepcional y que se plantearían o se aplicarían en ausencia de solución habitacional creo que el seño itxaso también en ese punto lo ha explicado perfectamente bien
nosotros en principio votaríamos eskerrik asko maneiro jauna nuestra enmienda aunque

tengo que decir que estamos de acuerdo básicamente con los dos primeros puntos pero no con el tercero nos parece que el tercero es llamar a la insumisión creo que los tribunales

respetados nosotros pensamos que las sentencias del tribunal constitucional también tienen que ser respetadas y de la lectura de ese tercer punto me parece que hay cierta llamada a la insumisión
en eso no estamos de acuerdo gracias eskerrik asko maneiro jauna

presentado por el gobierno de españa contra la misma nos parece importante que esta cámara el parlamento vasco participe en dicha causa y que se persone para defender la ley de vivienda en segundo lugar aun cuando la citada ley no haya sido promovida por el gobierno que también este tome parte en la decisión de personarse en el procedimiento abierto al efecto

participen en la defensa de la ley de vivienda porque creemos que tanto el parlamento como el gobierno deben salir en defensa de la competencia que en materia de vivienda le corresponde a nuestra comunidad autónoma

proponemos que con independencia a lo que resulte del recurso de inconstitucionalidad el gobierno siga profundizando en el sistema de ayudas para satisfacer la necesidad de vivienda de los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad este último punto entendemos que se engloba queda subsumido perfectamente en el punto tercero de la

acordada por los tres grupos es conocida nuestra postura sobre algunos aspectos de la ley de vivienda

pero ello no es óbice ni obstáculo para que coincidamos con otros grupos en la defensa de nuestra competencia en materia de vivienda

por eso apoyamos esta iniciativa dirigida a la protección a la conservación y al desarrollo

no solo lo apoyamos sino que creemos que con nuestra propuesta de personamiento del parlamento la reforzamos entendemos que este recurso de inconstitucionalidad es una actuación más dentro del ataque

recentralizadora practicada por el gobierno de rajoy en los últimos años que se concreta entre otras formas en otros modos en la permanente judicialización

por eso la personación en este recurso la entendemos como una defensa de autogobierno una defensa que nuestro partido viene realizando viene practicando históricamente

hemos de recordar el pronunciamiento expreso del lehendakari ante una pregunta oral en pleno realizado por el señor itxaso en el pasado mes de octubre

cinco razones que utilizará el gobierno en la defensa de la ley reclamando el pleno derecho que tiene euskadi para articular sus políticas públicas

del gobierno de españa que intenta coartar nuestras capacidad de legislar que atenta contra nuestro autogobierno

a tenor de sus manifestaciones satisfizo la preocupación del señor itxaso al respecto o más recientemente

ante la interpretación de la señora otamendi que da origen a la moción que hoy debatimos en ella

aprobada por este parlamento es una ley que el gobierno la hace suya que la desarrollará y que la aplicará toña sailburuak esan zuen etxebizitza legea

errekurritutako artikuluak indarrean jarraitzearen defentsa egingo duela para explicar nuestra postura ante esta iniciativa creemos que puede ayudar el viejo refrán

quien quiera defender el fuero es decir las competencias de euskadi nos va a tener a su lado

es decir reclamamos el derecho que tiene euskadi a hacer una mala ley el derecho que tiene este parlamento a equivocarse en su política de vivienda

incorporada en lo fundamental en la transacción acordada entre los grupos bildu socialistak y el nuestro propio es que además del gobierno que ya ha dicho que va a defender la ley

la administración general del estado debe entender que la postura mayoritaria de este parlamento es la de defender las competencias exclusivas en materia de vivienda

es la defensa del pacto político con el estado sancionado por la voluntad popular de euskadi manifestada en el año mil novecientos setenta y nueve finalmente dos cuestiones una agradecer a la señora otamendi y al señor itxaso su predisposición para alcanzar un acuerdo al respecto y también

desear suerte a los servicios jurídicos de esta cámara y décimos suerte porque entendemos que su profesionalidad está fuera de toda duda besterik ez

gracia señora presidenta arratsalde on guztioi bien no debatimos nada nuevo en esta cámara

debate novedoso y quizás esto es lo peor que la historia vuelve a repetirse con la misma bronca los argumentos algunos han cambiado un poco y los mismos objetivos de siempre y siguiendo el tono refranero que

ha dicho voy a decir un refrán que igual a algunos no les gusta porque es muy castizo muy español que es y lo que te rondaré morena porque no será la última vez

venga a esta cámara y los debates que ha habido eran previsibles que iban a producirse y las intervenciones de unos y otros también cuando se hace la interpelación efectivamente se había presentado el recurso pero no había pronunciamiento del tribunal constitucional y

y suspendiendo parte de la norma recurrida se han vuelto a oír los mismos argumentos

se opone a que los vascos tengan una vivienda quien se oponga a esta ley de vivienda

y no quiere reconocer los derechos de los vascos como dije el otro día algunos solo quieren hablar desde la demagogia

antisociales éramos antisocialespor señalar que esta ley no era una buena ley era una mala ley pero es que no este parlamento claro que tiene que tener competencias para hacer una buena ley o una mala ley pero tiene competencias para hacer una ley que no incurra

primer momento que en esta ley se incurría esa proposición de ley recogía el fallido proyecto socialista añadía un nuevo apartado

andaluz cuya exactitud ya ofrecía múltiples dudas también ofrecía dudas

dijo que era inconstitucional ese decreto bien la ley fue aprobada

del parlamento vasco se excedían en materias como el derecho a la propiedad en expropiaciones en facultades tributarias en régimen jurídico de las administraciones públicas nosotros es verdad que tenemos

no lo tenemos en la regulación del derecho a la propiedad como lo ha dicho reiteradamente el estado y como el tribunal constitucional

claramente de manifiesto y en esta ley como digo se incide en el estatuto de la propiedad que con arreglo al artículo treinta y tres de la constitución y con arreglo a la reserva competencial

corresponde al estado es decir existen materias reguladas por esta ley que inciden directamente en el estatuto del derecho a la propiedad y que cuya regulación le corresponde exclusivamente al estado por ello regulaciones como las del canon de vivienda deshabitada alquiler forzoso expropiaciones forzosas

y por ello una serie de artículos han sido recurridos y que no voy a reiterar hoy aquí porque ya la proponente los ha puesto de manifiesto se considera también que a través de estos artículos

y en el cumplimiento de los deberes constitucionales en materia de derecho civil

la imposición de multas y sanciones se hace sin ninguna graduación entre ellas vulnerando el principio de proporcionalidad y también en oposición a lo establecido en los artículos veinticuatro punto dos veinticinco y ciento cuarenta y nueve de la constitución se establece

basándose en un sistema de presunciones prescindiendo de los principios que rigen la responsabilidad penal o administrativa sancionadora en el ordenamiento jurídico español

el recurso pone de manifiesto que parte de los argumentos que se vertieron en esta cámara durante la aprobación y tramitación de la ley eran ciertos

y en el debate hubo grupos que ya los pusimos de manifiesto

le da igual que se infrinja preceptos constitucionales que no

detrás de la pancarta a eso no le gana nadie con lo cual también le da igual y más extraña bueno no extraña era previsible la postura

la que más perplejidad causa es la del partido nacionalista vasco porque cuando se aprueba la ley el propio gobierno vasco expresa las dudas sobre la seguridad jurídica por boca del señor toña

preguntado por la interposición del recurso que el partido nacionalista vasco había advertido en la tramitación de la iniciativa legislativa que esta ley podría ser recurrida ante el tribunal constitucional luego

sin embargo luego el gobierno vasco cuando se interpone el recurso verdad se rasga las vestiduras no pasa nada si con ello ustedes se contradicen ustedes han demostrado que son capaces de pasar por encima de sus propios argumentos porque el objetivo

el objetivo es el fuero y en ese objetivo en cargar contra madrid

ustedes sea cual sea la responsabilidad que tienen en esa bancada

les vale cualquier cosa para situar a madrid en el centro de sus críticas políticas aunque sea una ley que ustedes mismos consideraban una

pero como les digo han sido bastante previsibles porque les avala una larga y dilatada estrategia de confrontación política con

al que tantas veces recurren para no verse retratados en su propia responsabilidad en la que les corresponde para presentar su balance de gestión

victimismo político que es lo que mejor saben hacer como les digo en esta estrategia les vale todo

como les digo ningún reparo en ir contra sus propios argumentos contra sus propias posiciones expuestas en este parlamento y fuera de aquí

que soportaba la ley vasca de vivienda aprobada la misma que aprecia el gobierno central y que le lleva a plantear el recurso

que ustedes como les decía también apuntaron la posible inconstitucionalidad de la ley en esos debates que por cierto yo no he dicho no menosprecie esos debates el otro día señor itxaso repase mis palabras lo que le dije es que habían sido debates

filosóficos pero no solamente con relación a la constitucionalidad no allí debatimos también

que tenía en las competencias de las administraciones locales de las diputaciones de los presupuestos de las distintas instituciones debatimos sobre muchísimas sobre muchísimas cosas

pues bien como les decía en todos esos debates a pesar de que se planteó la inconstitucionalidad de la ley ahora parece que para el partido nacionalista vasco se han borrado todos esos argumentos y ahora se centra usted bien ha dicho en lo que hay que hacer y qué es lo que hay que hacer ir contra madrid

desgastar y criticar al gobierno central la verdad es que es un ejercicio de esquizofrenia política perdónenme que le diga porque clama al cielo que ustedes critiquen ahora al gobierno por poner

que por boca de parte de este gobierno también en su momento se puso encima de la mesa porque usted lo ha dicho lo importante es que

no lo importante es ir contra el gobierno central

tenían dudas jurídicas ustedes la rechazaron pero no pasa

ahora todo vale

son malas para quien no tiene intención de cumplirlas eso lo tengo más que claro lo que no son las leyes casi nunca

son perfectas las leyes lógicamente no pueden contener todas las previsiones sin embargo la que aquí se ha aprobado el año pasado en materia de vivienda creo que no se le escapa a nadie

dentro de lo que es el derecho autonómico comparado o que son políticas de vivienda

trata de entroncar con esa idea la ley de vivienda no se planteó por lo menos como grupo proponente ni para desafiar al estado ni para provocarle al gobierno de hecho quiero recordarle señora llanos

para recurrir en algunos de esos artículos fue aprobada como queda claro por unión progreso y democracia por euskal herria bildu y por el grupo socialista pero usted sabe

muchas aportaciones tanto de su grupo como del grupo nacionalista porque se trataba de llevar adelante un texto que efectivamente fuera lo más consensuado posible pese a que lógicamente va a haber discrepancias porque en lo ideológico lógicamente también se va a manifestar en una ley sectorial como es la ley de la vivienda yo no sé exactamente dónde ha escuchado usted señora llanos decir que si

no no eso entraba dentro de las posibilidades porque habían sido anunciadas porque realmente la ofensiva de recurso

y por lo tanto era de esperar sobre qué es constitucional y qué no es constitucional en un texto

afirmarlo porque la sentencia que recayó sobre el decreto de ley andaluz

votos particulares que razonan en contra del fallo y que plantean claramente que en aquel caso en el caso del decreto de ley andaluz había capacidad y competencia

legislar en esos términos por lo tanto plantearse a priori un veto a uno mismo por mor de una eventual inconstitucionalidad que como digo siempre queda sujeta a interpretación pues hombre eso no deja de ser una claudicación y una división intelectual si nosotros tenemos

es una competencia exclusiva lo que no ocurre en otros ámbitos sectoriales y si hablamos de vivienda solo por ley autonómica como decía antes se puede

y si la propiedad en este caso la de la vivienda tiene que cumplir una función social la ley tiene que delimitar la ley autonómica en este caso su función social

desde luego como digo en ningún caso fue la pretensión de llevar adelante un desafió al estado

sobre todo en orden a atender una necesidad y un derecho que como he dicho se ha visto conculcado no pocas veces y las razones que esgrime

el decreto de ley andaluz sinceramente nos parecen argumentos muy forzados porque llevándolos al extremo realmente podría vaciarse de contenido absoluto

la posibilidad de intervenir una vivienda existe de antes no la ha traído la ley de la vivienda le recuerdo la ley del suelo de la que también habla el informe del consejo de estado o siquiera cuando un ayuntamiento un municipio plantea una orden de ejecución a una propiedad

también y por que eso es posible y no es posible una ley que trate de asignar debidamente los recursos habitacionales
a las necesidades de la población eskerrik asko itsaso jauna mistoa

el señor itxaso parece de upyd explica todo muy bien y es así

lo explica perfectamente bien yo estoy básicamente de acuerdo con lo que plantea y con cómo lo plantea

mucho en los últimos meses nuestras posiciones fueron explicadas en la ponencia parlamentaria y a través de las enmiendas que nosotros presentamos

algunas medidas introducidas en esa ley que provocaron polémica que fueron incluso contradictorias pero como ha explicado el señor itxaso son digamos

a ese texto legal desde luego no para desafiar al estado señora llanos sino porque pensábamos realmente y seguimos pensando que se trata de una ley

útil para los ciudadanos y por eso dimos el ok no para meter

a madrid no para desafiar al estado sino porque pensábamos que era una ley justa y además estábamos convencidos y seguimos estando convencidos de que es una ley plenamente

equivocados pero a día de hoy seguimos pensando que todos los planteamos que se incluyen en esa ley son plenamente constitucionales por eso dimos

porque se establece el derecho subjetivo a una vivienda digna y adecuada porque plantea medidas que evitarían desahucios contra los ciudadanos y porque plantea que toda la vivienda pública

durante los últimos siete años el gobierno de españa plantea un recurso de inconstitucionalidad y el tribunal constitucional efectivamente suspende

razonable que este gobierno vasco puesto que hace suya esta ley aprobada por este parlamento decida presentarse

esto me parece que es perfectamente razonable y que este mismo parlamento respetando incluso la decisión del gobierno de españa

y respetando también lo que pueda decidir el tribunal constitucional me parece razonable que este parlamento vasco también se presente y plantee sus alegaciones para defender precisamente el texto con la idea de que es plenamente

de frenada me parece que en este punto puesto que la ley ha sido aprobada me parece razonable que nos presentemos

en todo caso nosotros lo que sí décimos es que vamos a respetar en todo caso lo que diga el tribunal constitucional respetamos la ley y respetamos los tribunales y respetamos sus sentencias a día de hoy pensamos que esta ley es plenamente constitucional por eso nos parecen razonables los dos primeros puntos de la enmienda

de esta cámara no así el tercero donde se insta al gobierno vasco al desarrollo y puesta en marcha de cuantas medidas e iniciativas sean precisas para la aplicación integral de la ley de vivienda pienso que hay que tener en cuenta qué es lo que ha dicho el tribunal constitucional y qué es lo que puede decir definitivamente en los próximos meses

me parecía que el tercer punto era una especie de llamada al insumisión

no lo voy a apoyar los otros dos puntos me parecen razonables no me parecen descabellados llegados a este punto en el que la ley de vivienda
por este parlamento y el gobierno vasco la hizo suya gracias eskerrik asko

eserlekutik egingo dut eta labur labur señora otamendi y también para el señor itxaso cuando he hablado

porque entendemos que es manifiestamente mejorable la misma y

y precisamente aquella gente nos entregaron unos documentos que hablaba de la mala ley de vivienda porque no resolvía sus problemas o sea que no somos nosotros los únicos que hablamos de una mala ley de vivienda también los afectados

se resuelva este problema señora llanos nosotros no nos hemos opuesto cierto que hemos hablado de que esta ley corre riesgo de que sea recurrida al constitucional y que tiene posibilidades de

pero nosotros no nos hemos opuesto por esa razón nosotros nos hemos opuesto por ejemplo al tema de la vivienda deshabitada porque lo hace de manera deficiente

sino que a nuestro juicio lo que hace es invadir competencias de los territorios históricos y lo mismo respecto a la expropiación del uso de la vivienda

esa es la cuestión nosotros presentamos como bien sabe una iniciativa al respecto cuando tramitamos la ley separando lo que es responsabilidad personal digamos particular

responsabilidad del sistema cuando uno decide contratar un crédito y existen ciertos riesgos de que no pueda pagarlo lo que no se puede pretender es que en caso de impago seamos todos los que sustituyamos su responsabilidad personal señor itxaso cuando el mercado se desboca y arrasa con todo con las pensiones con las

un sistema público que garantice que quite el miedo a esas personas por eso en definitiva

de la comunidad autónoma nos oponíamos a esta ley y respecto al tema de la recentralización

ahora no vamos aunque ya la señora otamendi ha apuntado que no solamente los recursos de inconstitucionalidad sino que a través de los recursos contenciosos también el estado

está cercenando permanentemente nuestro ámbito de decisión nuestras competencias

pero no es solamente que sea una cuestión del partido nacionalista vasco o de este parlamento si quiera si es que es un clamor entre toda la oposición y todas las comunidades autónomas inclusive las gobernadas por ustedes es decir que ese afán recentralizador

a los hechos me remito y por tanto hablan por sí mismos no es una cuestión de su invención del partido nacionalista vasco eskerrik asko

ahora puedo acabar bien señor itxaso aquí se ha dicho textualmente en la primera intervención por parte de la representante de bildu

estaba en contra de los derechos de los ciudadanos y si no lea después sus palabras que

pero la cuestión está en que hay determinadas cuestiones claro que en derecho las cosas son debatidas hay distintas posiciones por eso existen los tribunales

cuatro el derecho pues evidentemente no tendría mucho sentido pero hay cuestiones que claramente están invadiendo

andaluz de vivienda no es cuestión de que se tenga sospechas indicios no pero

es que en algunos casos era porque iba en contra de otros derechos constitucionalmente reconocidos y yo lo dije cuando se debatió aquí la ley si no queremos que exista el derecho de la propiedad

pero si existe y existe una colisión habrá que tener en cuenta los dos derechos y por cierto la expropiación forzosa señor

es una de las cuestiones en las que según el ciento cuarenta y nueve punto uno punto dieciocho es competencia exclusiva del estado por ejemplo pero si usted mismo lo ha dicho

y probablemente hay muchos visos de que el tribunal constitucional acabe declarando esos preceptos

no constitucionales usted mismo lo ha dicho y dice

lo que sale de este parlamento oiga aunque sea contrario aunque sea contrario a la constitución y yo claro

cuando una ley no me parece buena que es una mala ley eso no quiere decir que nosotros no hayamos dicho siempre que tiene que haber una ley de vivienda pero una buena ley de vivienda y esta no es una buena ley no es una buena ley y yo revindico por mucho que lo haya aprobado este parlamento

como alguna que vendrá dentro de poco aquí que se va a interponer tiene una enmienda a la totalidad porque se considera que ese proyecto

por mucho que la hay aprobado este parlamento la respetaremos porque sale de una cámara legislativa pero es

hacemos nuestra la ley aunque consideremos que sea una mala ley

pero es que lo hacen exclusivamente se lo he dicho en mi primera intervención porque aunque el señor

de aprobarse la ley de la posible inconstitucionalidad de la ley al día siguiente y en onda vasca el señor urkullu también de que en

el pnv ya había alertado de la posible inconstitucionalidad de la ley eso sí cuando se interpone el recurso todos a una como en fuenteovejuna todos rasgándose las vestiduras la obsesión

porque la utiliza desde el primero hasta el último de los consejeros de este gobierno es una expresión que ha quedado marcada a fuego como en el ganado es la marca que tienen todos obsesión recentralizadora

cualquier consejero se trate de la materia que se trate pero oiga

pero es que luego muchos de ellos el tribunal constitucional los declara que se tiene razón luego quien entonces cuál es la obsesión recentralizadora

en la regulación si se quiere se tendrá que cambiar la constitución decir que determinadas cuestiones a partir de este momento sean cuestiones que tienen que ser ejercidas por las comunidades autónomas pero si según la constitución su competencia exclusiva del estado y se regulan por parte de las comunidades autónomas

y eso no es una obsesión recentralizadora eso es observar la ley

que si no vamos yo me hubiera quedado corta en la crítica que ustedes le hubieran hecho al partido nacionalista vasco

todo le vale todo le vale todo en este clamor contra madrid

hacen lo que han estado haciendo siempre que es tapar que no aparezca que no se desmonte ese mito de la buena gestión del partido nacionalista vasco al frente de las instituciones porque

no tengo que dar cuenta de lo que yo hago y de lo mal que hago lo que yo tengo que hacer nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

emendakina puntuka por un lado el punto uno y el punto dos y por otro lado el punto tres

eta hala zioen bajo el título de ultima una revolución de horarios en gipuzkoa por el incremento de viajeros

en un doce coma cinco por ciento los últimos dos años es por ello que se ha decidido ampliar el servicio importantemente para finales de año beraz

decía tony judt en su libro de algo va mal que posiblemente

que el ferrocarril es el medio de transporte más civil hay otras características del tren que justifican su protección e impulso por parte de los poderes públicos es un medio respetuoso con el medio ambiente el que menos contamina

es uno de los más seguros y es sin duda el que mejor vertebra el territorio

arratsalde on guztioi en este punto que debatimos ahora tratamos la moción del grupo socialista en la que se hace una petición muy concreta al gobierno vasco se le pide que extienda el servicio especial nocturno que ya tienen al menos cinco tramos de la red de euskotren al tramo comprendido

con motivo del debate de la interpelación que dio origen a esta moción

la consejera señora oregi y el señor elola argumentaron

hoy no está aquí la señora oregi pero la señora juez la ha sustituido

hemos oído los mismos argumentos que dio la señora oregi hoy

sobre este asunto por nuestra parte solo nos referiremos brevemente a algunos aspectos que nos parecen suficientes para tomar una posición

bilbao hendaya llama la atención una circunstancia que queremos resaltar qué ocurre en esta línea

existen tres tramos diferenciados el primer tramo que cuenta con gau trena comienza en bilbao y termina

el segundo tramo entre zumaia y lasarte zumaia es la estación siguiente a deba

no hay servicio nocturno y este vuelve a aparecer en el tercer tramo que va desde lasarte hasta hendaya por qué

que se beneficiarían del servicio nocturno de fin de semana si euskotren atendiera la petición de esta moción

cuarenta y cinco mil habitantes por otra parte

situados en el primer tramo que va hasta bilbao que disponen del servicio nocturno suman cuarenta y seis mil habitantes más o menos

situados en la misma línea de euskotren en fin

únicamente al tramo urola kosta donostia todavía no nos han dado ningún dato comparativo con otros por ejemplo como suele bilbao bermeo o entre durango y

con esto no quiere decir que haya que quitarle a deba y a eibar el servicio

en su día para descalificar la petición que se hace en esta moción nos parecen

no estamos hablando de rentabilidades económicas sino de un servicio público que por otra parte como queda dicho anteriormente

creemos que en la consejería deberían preguntarse si en algunos tramos de ferrocarril no hay servicios porque no hay viajeros o no hay viajeros porque no hay servicios del tren eso es más o menos lo que ha dicho el señor elola también antes

no cabe la menor duda de que el corredor costero que se extiende al oeste y al este de donostia tiene una población autóctona importante a la que se añade otra foránea no solo en periodo estival que se consolida año tras año

del crecimiento económico del territorio guipuzcoano facilitar la movilidad es muy necesario para el desarrollo turístico en general y el transporte público resulta determinante en los aspectos de seguridad y sostenibilidad por tanto es importante que las instituciones

esto es lo que también queremos resaltar que la movilidad debe ser entendida por las instituciones como un servicio público además

urola kosta bajo deba y donostia los servicios especiales nocturnos de euskotren deberían jugar un papel fundamental para satisfacer una demanda de movilidad que es real así lo ven

políticos incluido el pnv a favor de disponer este servicio por tanto la moción del grupo socialista nos parece oportuna y la apoyamos la enmienda

y eh bildu no nos parece adecuada está equivocada

de una demanda constatada por los ayuntamientos de la zona eskerrik asko

en primer lugar quiero agradecer la intervención del señor michelena porque hemos coincidido prácticamente en todo lo cual quiere decir quizás seamos los dos los dos grupos los que mejor entendamos a la zona

y somos los que precisamente al margen del resto que tengan conocimientos o información conozcamos la realidad

en referencia ha dicho usted que hoy no ha venido la consejera pero la señora juez la ha sustituido muy bien efectivamente la ha sustituido tan bien que incluso ha dado muchísimos más datos que la consejera

las tenemos hechas y ya veremos si luego coinciden cuando veamos el acta y si coinciden y

porque coincidiendo con el señor michelena usted ha hecho una intervención

eta esaten du el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que estudie en el menor plazo posible y de forma coordinada con la autoridad del transporte de gipuzkoa

perdón me he confundido estoy leyendo la pnl que presentó el partido socialista

tres años más tarde presentan lo mismo hacer un estudio hay una diferencia

en su enmienda dicen que analicen en el menor plazo posible

en la pnl que presentó jesús zaballos dice que se estudie

y si no que me lo expliquen entonces salió

de eh bildu pero hoy no sé qué pasa

juez andrea bildukoi zuzendu zinenean

como lo ha manifestado la última resolución sesenta y nueve barra cinco de este año de la asamblea general de las naciones unidas titulada

al bloqueo económico comercial y financiero impuesto por los estados unidos de américa contra cuba que concluyó con ciento noventa y uno países a favor de la resolución